porque seguramente a nadie le cabe duda de que el tav es una apuesta estratégica ni a nosotros mismos que nos hemos posicionado en contra del mismo desde el minuto de arranque de la propia infraestructura

es que no existe un análisis riguroso que acompañe la armadura de esa infraestructura así se reconocía en el propio impacto en la económica de la comunidad autónoma del país vasco de la y vasca

se nos decía y lo decían directamente los profesores encargados de realizar dicho informe que solo se habían estudiado beneficios no costes es más

que no le hemos contestado mis disculpas por no haberlo hecho antes sobre si era un verdadero estudio coste beneficio es parte de un informe de beneficio puesto que

obviamente la otra parte no está aquí no hemos evaluado

este ha sido el informe que durante mucho tiempo el departamento del gobierno vasco correspondiente o competente con la materia que hoy abordamos ha venido

reiterando como elemento definitorio y elemento central en su defensa del tren de alta velocidad como proyecto sostenible como proyecto que

aquello que invertíamos y cómo lo íbamos a recuperar para el conjunto de la sociedad

del informe que se ha utilizado para justificar esa lectura

ventajas económicas fundamentalmente económicas que pudiera traer y lo décimos porque los propios datos que utilizaba y así lo reconocían también en la comparecencia son datos obsoletos son datos que se hacen en función

del dos mil ocho es un informe que se realiza en el dos mil doce utilizando los datos estadísticos sobre input output del dos mil ocho

es el año en el que empieza asomar la temida y maldita crisis que todavía hoy estamos atravesando y la que ha transformado la que ha mutado de manera significativa y directa no solo nuestro modo de vida no solo el modo de vida de los y las ciudadanas de este país sino del conjunto

arrojando cifras cada vez más negativas o decrecientes

sobre los volúmenes de mercancías a transportar sobre los volúmenes de capacidad o renta per cápita de los ciudadanos para poder disponer de sus recursos de su dinero y utilizarlo en uno u otro modo de transporte y como digo todo esto todo ese informe se realizó en un contexto marcado por los inicios de una crisis que ha afectado a nuestras vidas pero que también afecta el desarrollo y la viabilidad futura

y sin embargo la realidad es que desde entonces hasta ahora nada ha variado en la determinación absoluta de este gobierno del gobierno de gasteiz

definidos antes del inicio de la crisis definidos en los momentos de la gran bonanza económica donde parece que el dinero se reproducía por esporas

necesidad de tener una planificación de país muy elevada porque como todo lo que venía era positivo

para que el crecimiento se diera en uno o en otro lugar pero nunca para estimular el crecimiento más o incluso para prever contextos de decrecimiento económico como el que hemos vivido así se ha sostenido la inversión del tren de alta velocidad contra viento y marea

esa inversión cada vez se cobra más aversión esa inversión de recursos públicos

hacia un proyecto que le priva al conjunto de la ciudadanía de este país de más recursos para otras cuestiones porque también podemos ver como desde el año dos mil diez hasta la actualidad el peso

del gasto en el tren de alta velocidad de la inversión del tren de alta velocidad en los propios presupuestos de la comunidad autónoma vasca siguen siendo

otra serie de cuestiones yo no voy a empezar aquí a comparar cuántos colegios se podrían mejorar

cuáles son las demandas de mejora de muchas infraestructuras absolutamente necesarias para sostener

es más elevado o tan elevado como el de los países nórdicos yo no voy a hacer la comparativa de cuánto se podría mejorar la sanidad la educación u otros

con lo que se ha destinado al tav pero no puedo dejar de mencionar que desde el año dos mil diez hasta el año dos mil quince el volumen el peso real de la inversión

de la inversión del presupuesto nunca ha estado por debajo del cincuenta por ciento del total nunca teniendo que dejar el otro restante para la diferentes inversiones seguramente tan o más necesarias

en el año dos mil once podemos hablar de un cuarenta y cinco coma ochenta y ocho ahí sí por debajo del cincuenta por ciento pero el dos mil diez del sesenta y nueve por ciento

en el dos mil catorce del sesenta y nueve por ciento en el dos mil quince del sesenta y ocho por ciento así pues sí tenemos ya cada vez

pero seguimos sin saber cuánto va a costar mantenerlo y en una macro infraestructura como las del trazado de alta velocidad tan importante como que lo que va a costar

sobre todo cuando vemos la realidad no ya del país vecino porque por desgracia todavía somos parte de esa estructura cuando sabemos que en el estado español las líneas de alta velocidad están teniendo que ser subvencionadas o sufragadas con dinero público para que arrojen unas

menos lesivas para los ojos de la ciudadanía en lo que tiene que ver con el uso de ese transporte por el volumen de pasajeros y en lo que tiene que ver con el transporte de mercancías que es

es nulo incluso en la línea que se considera

nos parece que lo que habría que hacer es proponer desde ya desde ahora un análisis coste beneficio que la ciudadanía entendiera

del que se le priva poder disponer para otras cosas es utilizado para una macro infraestructura que va a arrojar una serie de beneficios

se deja para la imaginación o para el deseo para el deseo de quienes invierten esa cantidad de dinero de todos y de todas para satisfacer los deseos de unos pocos nuevamente porque en el propio informe del que he hablado y que arrojó o que fue motivo de la comparecencia de octubre del dos mil quince se nos decía que la tarificación estaba mas o menos estimada en función de dos parámetros el a y el b

sobre el informe que he señalado antes que era del dos mil ocho

se han variado como bien se ha señalado en esta cámara en ocasiones para incrementar el tiempo de duración del transporte o del trayecto entre las capitales y tampoco se tenía en cuenta la conectividad

y con la meseta con la capital de españa si lo prefieren que tampoco a día de hoy parece que vaya a ser definitiva y mucho menos posible en los próximos años

o ante ese cúmulo de dificultades o de despropósitos que diríamos nosotros nos gustaría conocer cuáles son los beneficios que alguien entiende que va a arrojar esto

que nos señalen los costes porque todavía se siguen produciendo sobreprecios y que nos manifiesten también los costes de explotación

porque en todo este proyecto como en otros muchos esto no es una cuestión exclusiva del tren de alta velocidad a su paso por la comunidad autónoma vasca asistimos a una triste paradoja de nuestros tiempos y es que resulta que los más

son los que más se benefician del dinero de todos y de todas porque acciona ferrovial acs las grandes empresas del estado español aquellas

plataformas y que impulsan incluso o quieren impulsar gobiernos

son precisamente las que se financian las que se enriquecen con el dinero público con el dinero de todos y de todas si tanta fe tendrían en el mercado libre si tanta fe tendrían en el liberalismo lo normal

sería que buscaran su beneficio en el mundo privado que buscaran su beneficio recurriendo a su capacidad de generar ilusión en torno a sus negocios y no

en torno al dinero público para enriquecer sus bolsillos y esto con ser preocupante porque es preocupante en la fase de construcción todavía torna más preocupante

ferrovial acciona que también tienen que ver mucho con la y vasca se están postulando ya no solo para seguir enriqueciéndose en la construcción

reconvirtiendo y se están postulando y posicionando como operadores ferroviarios ante la pérdida de monopolio o la pérdida de carácter único de operador que pueda tener renfe esa es la realidad que creemos que también tienen que conocer todos los ciudadanos y nos sorprende

que en este contexto el lehendakari entiendo que en representación del conjunto del gobierno vasco pida hacernos con toda la gestión presente y futura del tren de alta velocidad sabiendo como sabemos y así lo dice fedea por ejemplo que quizás

que este corredor el corredor del norte será el menos rentable de todos

si sabemos lo que está pasando en la madrid sevilla por no hablar de la del mediterráneo si sabemos que están teniendo que ser sobrebonificadas con

para que pueda ser usado por más viajeros y pueda parecer algo más rentable de lo que en realidad no es si además cargamos con esta realidad cuánto dinero público más tendremos que destinar para hacer que en el tav pueda viajar más gente a nosotros no nos salen las cuentas

también bruselas señala esta misma cuestión bruselas señala que el ejecutivo comunitario acusa a españa

han conseguido privatizar los beneficios y socializar las pérdidas a pesar de ciertos retoques positivos en la regulación

el trazado de alta velocidad en el trazado de alta velocidad de la y vasca

ni se recuperan los costes de inversión ni se recuperan los costes de explotación es por tanto un agujero

que soportar por eso la comisión europea recomienda que se hagan análisis de coste que se hagan informes o análisis de coste beneficio y lo que choca

sobre todo en la comunidad autónoma vasca donde con tanta celeridad y a veces

tampoco nos preocupamos de hacer análisis de informe coste beneficios y eso es realmente extraño sobre todo cuando tenemos en cuenta lo que nos ha pasado con otras infraestructuras de calado en este país cuando vemos lo que ha pasado con la supersur o con la

en todas esas infraestructuras ha ocurrido exactamente lo mismo ha habido enormes desajustes entre el coste inicial y el final y la

ha habido demasiado desajuste entre la demanda estimada la que justificaba la ejecución del proyecto y la demanda real la que finalmente utiliza el proyecto

de más recursos para mejorar la calidad de vida proponemos la siguiente propuesta

de la infraestructura y estudie desde un punto de vista monetario también el impacto en el bienestar de la sociedad vasca y que se presente

sí gracias presidenta buenos días a todas y a todos lehendakari señores consejeros

instar al gobierno vasco a elaborar mediante un equipo de investigación independiente un análisis de coste beneficio de la y vasca y que ese estudio se presente en este parlamento

vaya por delante que no me parece una propuesta disparatada no votaré en contra de ella en todo caso preferimos mirar hacia delante y defender y votar la enmienda de upyd por las razones que voy a explicar y con el objetivo de que en el futuro

errores cometidos en el pasado a estas alturas del partido creo que es una evidencia que en el conjunto de españa se llevó a cabo durante años una producción irresponsable de infraestructuras

líneas de alta velocidad sin pasajeros estaciones fantasma soterramientos millónarios aeropuertos sin aviones carreteras sin vehículos

o edificios faraónicos sin función reconocida todo ello a mayor gloria del partido político de turno y sus retos electorales el alcalde corrupto o el mandamás local como consecuencia de este proceder irresponsable impulsado por los principales partidos políticos españoles españa se situó

y del dispendio de dinero público del paro del ridículo y de la corrupción en relación a la alta velocidad podemos dar algunos datos españa tendrá en poco tiempo cuatro mil kilómetros en líneas de alta velocidad más que francia estados unidos o alemania

le supera en el mundo quince millónes de euros se calcula que ha costado de media cada kilómetro de la red este precio se eleva considerablemente en euskadi veintiocho ciudades españolas la mayoría capitales de provincia tienen servicio de ave las próximas en sumarse serán burgos castellón y granada más de diez mil millónes es la deuda que arrastra el gobierno de españa por las obras del ave en dos mil diecisiete sumará

treinta y uno millónes de pasajeros sumó la red de alta velocidad española en dos mil quince supone un incremento de más del cinco por ciento respecto al año anterior pero no es suficiente

de explotación es obvio que todos los transportes públicos son deficitarios otra cosa es que sean socialmente necesarios y a la vista está que muchas obras de las que se han llevado a cabo no lo eran ni lo son

socialmente necesarias a las electoralmente rentables que a veces por cierto ni eso efectivamente la y vasca

de españa nosotros apoyamos la y vasca y queremos que las obras se finalicen en el plazo más razonable posible sin que esto como hemos venido diciendo suponga atender o dejar de atender mejor dicho las necesidades más urgentes de los ciudadanos

tuviera que tomarse ahora bastantes cosas se harían de modo diferente por otro lado tampoco podemos decir que la construcción de la y vasca no fuera profusamente debatida en euskadi sí fue debatida y los principales partidos políticos la apoyaron en su momento

a día de hoy iniciada pensamos que debe ser finalizada de la mejor manera posible paralizarla supondría unos costes superiores que continuar adelante con ella y terminarla se trata en todo caso de no repetir los errores y por eso proponemos la enmienda que proponemos y que votaremos lo que proponemos nosotros es que este parlamento inste al gobierno vasco y al gobierno de españa a elaborar y llevar a cabo un análisis de coste beneficio y de viabilidad económica financiera medioambiental y social para cualquier inversión pública

con exposición pública obligatoria de estos estudios y de los criterios seguidos para su elaboración y con periodo público de alegaciones de modo que la necesidad de dicha infraestructura deba razonarse y justificarse desde un punto de vista económico político social y medioambiental como condición indispensable para llevarla a cabo

pueda ser perfectamente explicada a la ciudadanía y dados los argumentos suficientes para defender su puesta en marcha seguro que de este modo no podremos solucionar los errores cometidos en el pasado pero al menos impediremos cometer en el futuro y de este modo hacer un uso apropiado de los recursos públicos no se trata de parar obras que ya están en marcha se trata al menos de no iniciar nuevas obras cuya necesidad no quede perfectamente demostrada

de hacer un buen uso de los recursos públicos se trata de anteponer los intereses reales de los ciudadanos a los intereses de los partidos políticos o de determinadas empresas se trata de invertir con rigor

y con todas las garantías priorizando en todo caso las necesidades reales de los ciudadanos priorizando en todo caso la inversión en educación en sanidad en dependencia y en inversiones realmente productivas en inversiones productivas puedan ser disfrutadas y utilizadas por la mayoría de ciudadanos y no solo por unos pocos esta es por lo tanto la enmienda que hemos presentado y que

helburua gure erkidegoa orain arte bezala atzean ez gelditzea da existen informes por ejemplo el de adif un informe del año dos mil nueve hay que hablar de todos los informes no solo de los informes que avalan o que nos interesan para cubrir nuestras

el dinero destinado a este proyecto además es indisponible por lo tanto analicemos todos los informes y no solo los que avalan un interés

buenos días señorías señor matute

hace años como dice usted en la justificación de su propuesta algunos partidos políticos que representaban a muchos ciudadanos hicieron una apuesta estratégica como fue el proyecto del tren de alta velocidad una puesta estratégica que ustedes no hicieron muy legítimo pero

la rechazaron frontalmente pero no consiguieron evitar que prosperara porque ustedes no representaban a la mayoría social y política de este país

en vez de asumirlo lo que se han dedicado con ahínco es a perjudicar la consideración social de esta infraestructura

y de paso poner todas las trabas de las que han sido capaces para ponérnoslo

a quienes sí habíamos hecho esta apuesta estratégica y teníamos una mayoría política y social para llevar adelante que ustedes rechacen el tren de alta velocidad no me parece mal

lo que me parece mal es que deliberadamente y lo están haciendo mucho y lo constato

cada dos por tres es que estén dedicándose a

sobre la sociedad vasca una imagen de esta infraestructura a su medida

que este parlamento no se lo va a financiar no debiéramos

en su iniciativa es que no haya habido debate económico y técnico

yo es que nunca hubiera sido tan categórica en una justificación

al revés creo que hemos debatido mucho al respecto dentro y fuera de las instituciones ya solo en esta legislatura que todavía no ha terminado en esta que tampoco es en la que más

y la puesta estratégica es mucho anterior cien iniciativas

una cifra menor entonces qué hemos hecho perder el tiempo en este parlamento

siempre y cuando se debata de esto que estamos perdiendo el tiempo señor matute entre las últimas iniciativas además propuestas por su grupo cuenta usted a petición suya de un informe sobre el impacto económico en euskadi de la nueva red ferroviaria vasca

sobre la rentabilidad económica y social del tren de alta velocidad como las del profesor rus y el profesor hoyos necesita de verdad corroborarse más en su negativa y en su rechazo al tren de alta velocidad o acaso contempla que en algún estudio

expertos independientes a los que usted les confiere una autoridad

espero que sean profesionales porque independientes si eres profesional si no

porque somos todos tendenciosos profesionalmente me imagino que habla de profesionales

equivocado en algún término y a lo mejor hay algún estudio que me hace vamos eso es política ficción

que no esté a la medida de esa tesis no le vale no le vale lo que usted quiere es cargarse de razones

análisis sería uno más a añadir al inventario de su esfuerzo político ideológico para rechazarlo pero con el aura de que es

no lo quiere realmente para considerar o reconsiderar nada que usted ya no defienda

segura de que usted no necesitaría ningún estudio para defender lo rentable socialmente que le ha salido a los catalanes todo el dinero que se han gastado las instituciones catalanas gobernadas por los nacionalistas en la consulta y el proceso o qué ese dinero es súper rentable vamos ese está muy bien ahí y no estaría mejor en colegios etcétera sí sí le hablo a usted porque es podría

por ello creo que instar a estas alturas al gobierno vasco a realizar un análisis coste beneficio es anacrónico yo no digo que no sea interesante

lo realizara pues a mí me gustaría conocerlo pero es que no lo ha hecho me he revisado la bibliografía y con todo lo interesante que pudiera ser

no sé por qué motivo a la comunidad científica no le interesa especialmente

es más tienen que remitirse constantemente

muy de rigor pero vamos un estudio del noventa y tantos que es el único que se cita constantemente

pero es que estamos en otra fase estamos en otro estadio el reciente informe de

ese se lo ha saltado con todo lo que le interesa a usted la investigación ese no lo ha mencionado

es más caro que continuar con el proyecto el debate al que ustedes nos quieren retrotraer en esta y en otras instituciones

cómo optimizamos la intermodalidad cómo conseguimos recuperar los espacios urbanos en las capitales

estamos en eso no estamos en lo otro me sorprende que para defender la

hable de lo obsoleto que se queda el informe de impacto

resultar hoy que no quede obsoleto a medio y largo plazo por eso nosotros vamos a rechazar esta iniciativa por tres motivos porque

social de esta infraestructura de alta velocidad en euskadi eso es su primer objetivo el segundo porque es anacrónico

el cuéntame de la política y porque ustedes en el fondo no lo necesitan no lo necesitan no les hace falta

y me sorprende sinceramente que en el ámbito universitario todavía no se haya

a nivel legal además no es un análisis preceptivo ni en españa ni en el país vasco ni para

tampoco se hace yo lo que le animo señor matute es que en esas dobles jornadas que ustedes organizan con expertos que

y en actos de bildu por la tarde les animen a que desde sus cátedras o desde sus púlpitos o desde donde estén hagan este estudio se lo den a ustedes en una jornada y que por la tarde vengan al parlamento y nos lo cuenten a los parlamentarios

el orden de los factores no alteraría la suma el presupuesto solo bien

su intervención sinceramente me ha parecido ya el enésimo alegato ideológico

alegato que no compartimos y por el que vamos

estuvo defendiendo el tren de alta velocidad o de velocidad alta déjeme acabar no me interrumpa

que sino la señora presidenta luego me va a cortar y ustedes planteaban en vez de la y la u

me quiere decir usted en base a qué estudios económicos

digo yo lo que no entiendo es que cuando su partido cogobernaba con el lehendakari ibarretxe con su compañero el consejero señor madrazo

porque usted sabe que el tav la y vasca ha estado siempre acompañado de estudios de todo tipo y que se

y medidas correctoras donde se detallan todo tipo de afecciones al medio natural también se deben tener en cuenta las medidas correctoras que a lo largo de su trazado de producían en la economía y en el paisaje urbano e incluso en los aspectos sociológicos

de los núcleos de poblaciones afectadas incluso se contempla la cría yo qué sé qué del visón europea

porque sí porque eso también les preocupara posiblemente lehen aipatu duzu

usted estuvo en ese gobierno compartía ese gobierno con su compañero y habla de opacidad ahora

usted sabe perfectamente que mucho antes de aportar por este trazado ferroviario se realizaron numerosos estudios sociológicos sobre movilidad conectividad y transporte

entonces cómo puede decir en su justificación escrita que no se haya realizado ningún verdadero estudio de coste beneficio

infraestructuras antisociales aipatu duzu eta nik galdetzen dizut se refiere también a la autovía de leizaran que la izquierda abertzale combatió a sangre y fuego y hoy por hoy estoy convencido que ni uno sube por azpiroz cuando va a lekunberri o a pamplona estoy convencido

que hoy en día es un trasvase de camiones de basura hasta cantabria con el aumento de coste que nos supone a todos los guipuzcoanos en la cuestión de la basura que ha sido su primer objetivo en gipuzkoa

pues sí eso es euskal herria bildu y ahora está atacando al resto de que somos apoyamos a infraestructuras antisociales

no se preocupe porque no me ha molestado si he gesticulado ha sido porque me ha parecido muy interesante su reflexión altamente interesante

y en política más la introspección personal yo le prometo que voy a hacer una introspección personal sobre cuál ha sido mi posición en el tav pero sé que el señor lehendakari y sé que diferentes miembros de la bancada del partido nacionalista vasco

pero ya que hablamos de introspección personal y ya que usted decide no hablar del análisis de coste beneficio de hablar de otras cosas yo también le invito a usted a que haga introspección personal a que la haga no ya

hágala incluso de la ultima formación política en la que estuvo antes de estar en el partido socialista que lo que se defendía entonces y lo que se defiende ahora sin tener que mencionar sin tener que mencionar aspectos escabrosos de la actualidad política ha cambiado también en usted pero yo le voy a dar una oportunidad la que usted parece que no da a nadie se la voy a dar probablemente si nos vamos conociendo más nos daremos cuenta de que a lo mejor

torticeros porque eso es lo que me ha parecido su intervención se lo digo con respeto más que entrar al meollo de la cuestión usted hablaba de la u vasca es el único elemento digamos de argumentación política en lo que tiene que ver este debate que usted ha empleado sí que tenía la u vasca un análisis

político y un informe económico un informe económico de rentabilidad social económica y medio ambiental realizado por profesores de universidad

algunos creo que incluso en algún momento decidieron apoyar algunas de sus aventuras políticas

después se lo paso pero no voy a perder más tiempo insisto yo no voy a entrar en ese debate

porque creo que no aporta nada a esta cámara y porque yo no tengo nada que ocultar y porque yo no sé

tan ejemplificantes y tan edificantes como para que nos recreemos en ellas

a la representante del partido popular ha comentado varias cuestiones que me parecen importantes una era la de standard poors yo tengo aquí un informe de standard poors del catorce de febrero creo que era

la cosa se pone todavía más interesante porque dice que en el penúltimo párrafo reconoce que españa ya cuenta con una buena dotación pero que es preciso prestar atención a sectores como las dotaciones relacionadas con el agua luego dice que no se pueden condicionar las

no es la mejor carta de presentación para echar por tierra esta petición que hacemos análisis coste

es el argumento que dice que es más caro pararlo

ahora no están muy de moda es cierto en valencia para la fórmula uno ahora

los modos y procederes de la política del partido popular en valencia y claro nos habla también del informe de renfe del informe de adif perdón hombre

y también es importante la fecha en la que lo hizo y usted lo ha señalado pues no es muy actual pero

porque es quien gestiona toda la realidad de la alta velocidad pero es que claro también tiene un ejemplo en cataluña con dos imputados por chanchullos en el ave que tampoco sé si es la mejor fuente en la que beber y lo que no puede ser es una cosa y la contraria o sea no puede ser que presentemos cien iniciativas y que

no puede ser que tengamos una fijación casi obsesiva por hacer un debate ideológico y que no hayamos hecho un debate ideológico yo creo que una de las dos personas no ha entendido lo que hemos planteado y con todo el respeto creo que ha sido usted señor elola y para finalizar

con el planteamiento del partido nacionalista vasco con lo que ha venido a plantear

claro que hay opiniones a favor y en contra lo que yo estoy diciendo es algo muy sencillo y yo creo que lo entiende toda la ciudadanía

tiene bastante sentido común es decir cuando vamos acometer grandes infraestructuras

es absolutamente necesario que sepamos que todo eso que nos va a costar tanto y nos va a impedir poder destinarlo a otras cosas va a tener algún tipo de rentabilidad

mi dinero para privarme de cosas en el presente y en el corto plazo en algo

me va a reportar algo o si por el contrario es un saco perdido y eso no se ha hecho con esta obra

que no haya informes no he dicho que no haya gente que se ha posicionado a favor o en contra es evidente

la comisión europea lo está reclamando cada vez con más insistencia para obras de este calado y más en un contexto como este de crisis cuando los recursos cada vez son más escasos

que ha habido irresponsabilidad por supuesto que sí y que el negocio
se torna o antoja ruinoso también eskerrik asko matute jauna

de upyd porque ciertamente los diferentes grupos han planteado argumentos para votar en contra de la iniciativa de eh bildu

digamos que respetamos pero que son argumentos que no valen para la enmienda de upyd que creo que es una enmienda que

ha planteado por lo tanto me gustaría que en este segundo turno ustedes nos explicaran las razones por las cuales votarán quizás

la enmienda de upyd qué es lo que no les gusta de esa enmienda de upyd porque el señor elolaúnicamente ha dicho que se trata de una enmienda que es poco

y se especifica exactamente bien qué es lo que queremos que antes de poner en marcha una gran infraestructura en euskadi o en españa se haga un análisis riguroso de coste beneficio tal como realizan y llevan a la práctica los países más avanzados del mundo que por cierto todo llegará y llegará también a euskadi

un análisis coste beneficio para llevar a cabo cualquier tipo de infraestructura

llegará y aquí lo recordaremos nosotros ya digo se trata de pedir al gobierno vasco y al gobierno de españa

de un análisis coste beneficio y de viabilidad económica financiera medioambiental y social para cualquier inversión pública en infraestructuras que pretendan llevar a cabo para que quede perfectamente demostrado que esa infraestructura es necesaria y efectivamente

cosa que en el pasado ustedes todos no han hecho nunca y puesto que ustedes no lo han hecho nosotros lo que pedimos es que de cara al futuro se empiece a hacer

cómo han actuado ustedes en el resto de españa han actuado correctamente se sienten orgullosos

ustedes que se ha debatido suficiente en el conjunto de españa en relación al tren de alta velocidad piensan así esto de verdad piensan ustedes que no se han cometido errores y errores de bulto que han provocado dispendio inmenso de dinero público piensan ustedes que se han hecho bien las cosas

piensan ustedes que el tren de alta velocidad y cómo se ha desarrollado durante todos estos años responde a las necesidades reales de los ciudadanos lo piensan de verdad se han hecho estudios de coste beneficio para llevar a cabo esas infraestructuras responden a las necesidades reales de los ciudadanos

lamentablemente mal a lo largo de tantos años en el conjunto de españa

y al menos pongamos encima de la mesa la necesidad de analizar mejor estas obras que ustedes

tan sencillo como eso efectivamente habrá detractores del tren de alta velocidad y habrá quien defienda el tren de alta velocidad lo que se trata es de tener

para actuar con la máxima transparencia y esto es lo que ustedes no quieren hacer ustedes no quieren poner encima de la mesa esos estudios ustedes no quieren que se realicen esos estudios ustedes no quieren explicar qué es lo que se ha hecho

y ustedes lo que nos quieren es efectivamente que de cara al futuro se siga actuando de esa manera tan

lamentable decía el señor elola hemos apoyado infraestructuras antisociales si usted pertenece al partido socialista obrero español

líneas de alta velocidad sin pasajeros estaciones fantasma soterramientos millónarios aeropuertos sin aviones carreteras sin vehículos

eso es lo que ustedes han hecho a lo largo de los últimos años en españa lo han hecho por lo tanto

el dinero público a sus propios intereses de partido al alcalde corrupto de turno en lugar de destinarlos a las necesidades reales de los ciudadanos y esto

que esto es efectivamente así y ustedes en relación a la iniciativa de eh bildu la califican de anacrónica fuera de plazo

estamos en otra fase en fin este debate ya se ha superado vale pero es que la enmienda de upyd lo que plantea es mirar al futuro esos estudios de coste beneficio a partir de ahora para no repetir los errores del pasado y ciertamente llama la atención la falta de autocrítica de todos ustedes y la negativa a impulsar esos estudios que como digo antes o después porque tantas cosas están cambiando en españa en los últimos meses

últimos días que antes o después se llevará a cabo porque esto lo realizan todos los países desarrollados del mundo y evidentemente

la enmienda del partido nacionalista vasco únicamente recordarles que esto ya se ha aprobado en este parlamento en otras ocasiones y no aporta absolutamente nada al debate el asunto es queremos hacer las cosas bien a partir de ahora es necesario presentar un estudio de coste beneficio para justificar obras de infraestructura que suponen millónes de euros de dinero público nosotros pensamos que sí ciertamente

sí se entienden ustedes no quieren realizar esos estudios ciertamente lamentable por lo tanto su posición salvo que finalmente opten por votar la enmienda de totalidad de upyd que como digo es razonable coherente y mira al futuro

eskerrik asko eta egun on berriro apuesta de futuro beneficio social rentabilidad social esas son las claves

son datos mucho más generales berriro diot orain arte

a la confusión y lo que pide upyd ya está recogido para los proyectos futuros pero tenemos que recordar

esta casi realidad data hace muchos años entonces

badezakezue azaldu mesedez incremento de la economía motor turístico dinamizador de las relaciones económicas y comerciales la y vasca reducirá en un setenta por ciento el nivel de emisiones contaminantes

aumentará el ahorro energético estos también son datos derivados de sendos análisis exhaustivos que avalan

entonces vuelvo a repetir hay que analizar todos los informes y todos los estudios y no solo contar lo que a nosotros nos conviene vuelvo a insistir apuesta estratégica

gracias señora presidenta señor maneiro

la iniciativa de bildu y en eso me he centrado es más creía haber tenido la deferencia de pasar por alto su enmienda

y tiene un cierto egocentrismo parlamentario y encima nos emplaza a ello

su enmienda sí más o menos con ese texto se debatió en el congreso de los diputados no hace tanto seguro que el señor erkoreka igual lo recuerda a iniciativa

para hacer esto que usted está pidiendo y no le quiero ni explicar

pero los sapos y culebras que lanzó el señor su correligionario martínez gorriarán para oponerse a esa iniciativa entonces digo yo a mí me sorprendió

como en fin hoy no va de esto y va más de rechazar la suya y estoy de acuerdo con lo que plantea la enmienda del pnv lo pasaré por alto pero me emplaza usted abiertamente

se lo iba a ahorrar pero ya que me emplaza se lo digo es que

que en fin es que fue su compañero de

es que no fue una intervención tranquila es que fue vamos no sé si es el estilo del congreso pero me llamó la atención hasta que punto se pueden decir barbaridades

curioso curioso sin más entonces no es que me parezca tampoco que la rechace frontalmente su enmienda simplemente que me gusta la del pnv entre otras cosas porque es que tampoco

cuando se presentó la iniciativa yo no quería aceptarla pero tampoco se me ocurría cómo enmendarla simplemente

que ya está asumido por todos y no hay inconveniente

no tenía mucha razón por lo menos no es coherente por lo menos no es coherente y bueno yo creo señor matute

tampoco tengo antológicamente nada en contra para que se haga un informe de esas características

científica y universitaria a que lo hiciera y si fuera así

hasta yo misma pediría la comparecencia de quien lo haga para que viniera hablar pero anacrónico me concederá que sí es

retrotraernos a un informe que se podría haber hecho quizá

al inicio de todas las conversaciones y debates cuando todavía todo era un proyecto menos que embrionario a lo mejor hubiera tenido más recorrido pero yo no estaba en este parlamento y usted

y ya se lo ha recordado el señor elola que yo tampoco tenía intención de

y tampoco le he visto que haya puesto mucho interés en neutralizarme

concretamente con cataluña se ha ido por la derivada pero le insisto hay otros temas

social y económica de la consulta y del proceso y fíjese si ese dinero que es muchísimo

para gastárselo en otras necesidades de los catalanes gracias eskerrik asko ruiz andrea

eskerrik asko berriro ere batzarburu andrea en primer lugar me refiero

usted ha dicho que no entiende por qué no apoyamos su propuesta yo le he dicho que la del pnv concreta más porque la del pnv habla de un proyecto que ya está en marcha y está casi a finalizar luego entonces es más completa

argumentando lo que ha argumentado no apoya la propuesta de eh bildu porque al final están hablando de coste beneficio

y que no pasa nada no le va a pasar nada mire nosotros apoyamos muchas propuestas de ellos

el jugar a la política el hacer política la transversalidad que es interesante que aquí estamos todos para eso el señor matute ha hablado de introspección personal refiriéndose a mí claramente

político mire usted yo no tengo ni un problema de hablar de mi árbol genealógico político en absoluto públicamente he hablado muchas veces

sé lo que he sido lo que soy no sé lo que seré quizás usted sí quizás usted diez años más siga ahí yo no

si es que ustedes solucionaran su problema en su grupo me refiero en cuanto a su árbol genealógico

hablaríamos en este foro de otra manera y hablaríamos en igualdad de condiciones cosa que hoy no ocurre usted ha hablado de que ustedes apoyaron en su día

era un tren de velocidad alta apoyado por algunos miembros de la universidad vasca pues estudios pero mire usted estudios hay de apoyo y en contra

y eso qué es parcialidad o imparcialidad

económico por miembros independientes yo no sé si hay independientes pero bueno y

aquí hay un estudio que presentaron en comisión recientemente allá por septiembre presentado por un miembro de la upv javier fernández macho

la descalificó porque no era lo suficientemente porque no hablaba de lo que exactamente usted pedía pero este señor dijo ya que se ha referido a él dijo a nivel personal yo creo que en nuestro entorno socioeconómico es una necesidad incluso un derecho porque no encuentro en muchos sitios industrializados zonas tan industrializadas como euskadi

una carencia de medios de transporte ferroviario como la que aquí tenemos no puedo tener

pero es que es la que tenemos él habla de la necesidad es la que tenemos y desde luego le reto a usted a que presente aquí los datos

destruir todo que seguir continuando yo nosotros creemos que en este momento lo interesante es y tenemos que apostar por la finalización cuanto antes

iniciada su marcha tengamos los beneficios que corresponden habla también de un tema que usted no ha hablado el señor macho y nosotros también

de la reducción de la siniestralidad no ha hablado nadie aquí de ese tema

con esta red ferroviaria entre otras vamos a reducir la siniestralidad al margen de otro tipo de mejoras económicas medioambientales que hemos hablado antes esas y desde luego los que apostamos por lo público normalmente no es para tener un beneficio económico es para dar un servicio a los ciudadanos

y luego ha hablado hemos hablado de que es un tema político claro que es un tema político azken egun hauetan

ekimena aurkeztu eta aldezteko sí gracias presidenta y buenos días
a todos efectivamente el tema de garoña es un tema sobre el que se ha debatido muchísimo en los últimos años y también en esta legislatura

en la reapertura o no de la central hace unos meses debatimos sobre la posibilidad o no de poner un cementerio nuclear

la central nuclear y hoy lo que nos trae aquí es el último pleno del consejo de seguridad nuclear

de enero por tanto hoy volvemos a traer a esta tribuna una preocupación de los alaveses pero también de los vascos

haya un gobierno de españa que deje de desoír el clamor social y que aplique el sentido común el cierre de las centrales de más de cuarenta años como es el caso

hoy seguro que alguien que nos escuche pueda pensar que vamos a volver a traer un tema repetido hasta la saciedad en esta cámara es verdad lo hemos repetido muchas veces y es un asunto reiterado y reiteradamente hemos pedido lo mismo y reiteradamente el gobierno del partido popular

un gobierno del partido popular en pleno derecho y ahora un partido popular en funciones pero esta vez además el gobierno de rajoy ha utilizado la puerta de atrás sus potestades administrativas para reabrir lo que su antecesor paró y a quien lo que aquí discutimos le pueda parecer inútil le pueda parecer un simple

habrá que decirle que cada vez que esta cámara ha levantado la voz lo ha hecho de la mano de la sociedad a la que representa y cada una de las ocasiones ha contribuido

que esconden intereses ocultos porque todavía

a su etapa negra se ha querido escudar en informes técnicos del consejo de seguridad nuclear para amparar lo que es una neta voluntad política

la decisión es política no técnica porque podemos pensar lo que sea del consejo de seguridad nuclear

deben de dejar de estar supeditados a directrices de partidos políticos plenamente de acuerdo pero no venimos a discutir el último informe del consejo de seguridad nuclear

en que seamos los partidos los que determinemos qué debe de aprobar o no este consejo

lo que ha decidido el partido popular porque aunque el consejo de seguridad diga que se puede abrir la voluntad mayoritaria

y ahora también la mayoría del congreso de los diputados es poner fin a la prolongación artificial de esta instalación y a empezar a poner las bases sobre fórmulas de producción energéticas

como digo es una posición política y no una posición técnica así que no hará falta repetir lo que ya hemos dicho en otras ocasiones que garoña no es imprescindible para el suministro eléctrico

interés económico para quien impulsa la central y que no queremos un cementerio nuclear allí no hace falta que lo repitamos porque por mucho que instemos al gobierno de rajoy da igual la mala noticia para ese gobierno es que ya no tiene tiempo de cumplir su última amenaza referida a las instalaciones de garoña

del consejo de seguridad nuclear ha retrasado el tema de la decisión y si hay un nuevo ejecutivo el cinco de marzo ese día comienza la cuenta atrás definitiva de la central

tengamos que poner toda las cautelas que el gobierno vasco no baje la guardia

en el ejecutivo en funciones en contra de lo que aquí vamos a volver a decir y que ejerza todas las actuaciones que esté en su mano sin excepción para impedir que el pp deje una herencia envenenada

el mismo objetivo es legítimo defender la reapertura de garoña

en lugar de por otras alternativas menos agresivas porque todo lo que se defiende con la palabra puede ser legítimo quien lo defienda que lo diga y quien no que sea consecuente por parte de los socialistas vascos vamos a mantener la misma posición en euskadi y en el congreso de los diputados donde ya hemos presentado una iniciativa parlamentaria los parlamentarios en vitoria y los diputados en madrid defendemos y hemos defendido lo mismo

los del partido nacionalista vasco tengo dudas con lo que van a hacer los del partido popular que aquí dicen una cosa

otras aun siendo vascos los que hablan del tema esto de hoy no es para quedar bien con nadie no es para no tener que escondernos cuando los ciudadanos vuelvan a pedir en la calle este cierre

no es para quedar bien ni para preparar ninguna próxima campaña electoral porque los socialistas estamos en otro escenario no estamos ahí estamos viendo a ver si es posible que se empiece a trabajar ya

y entre otras cosas el cierre de garoña sea una de las primeras decisiones por eso seguimos manteniendo que a partir del día cinco comienza la cuenta atrás nos gustaría que la enmienda transaccional que hemos firmado el partido nacionalista vasco eh bildu y el partido socialista sea refrendada por el resto de grupos parlamentarios porque hemos intentado en esos seis puntos recoger todas las peticiones que a través de las enmiendas a la totalidad proponían todos los grupos parlamentarios

incluido al final para intentar tener una vez más o

la unanimidad de todos los grupos parlamentarios en contra de la próxima
apertura de garoña que es lo que quiere hacer el partido popular nada más y muchas gracias eskerrik asko rojo andrea

originalidad y por la innovación en la confección de iniciativas parlamentarias en esta cámara

en el mismo sentido que la actual por enésima vez en las mismas claves debatimos hoy sobre santa maría de garoña como empresa de productos nucleares

en esta cuestión es decir yo creo que ya no procede más el debate sobre la cuestión el parlamento ya se ha expresado en relación con qué

ya ha encargado al gobierno vasco sus posicionamientos

impugnar y pedir que se impugne cualquier decisión de reapertura también integrarse promover comisiones de estudio de expertos apoyar

esto señora rojo está decidido por esta cámara volvemos otra vez no volvemos otra vez

a favor de ese cierre en las declaraciones parlamentarias de cinco de junio de dos mil catorce diecinueve de febrero de dos mil quince ahí están y esa es nuestra posición también estábamos básicamente de acuerdo el diecinueve de noviembre pasado ustedes no nos dejaron votar por puntos y bueno pues en cualquier caso

ya está ahí usted decía que nosotros en el grupo popular podemos decir una cosa

pero ustedes dicen una cosa e hicieron otra esa es la verdad es lo que hay que decir ustedes

prorrogaron la vida útil de la central nuclear de santa maría de garoña cuando podían

fruto de aquella magistral decisión de gobierno socialista pues ahora estamos con ese

de su grupo en este tema bien brevemente en la enmienda de transacción no dice nada nuevo ahí está

de la mayoría de la sociedad vasca y particularmente alavesa contrarias a la reapertura de la central nuclear santa maría de garoña exige el cierre definitivo de la misma

el parlamento vasco insta al gobierno de españa a cumplir en su integridad la resolución

también en esta cámara por la mayoría parlamentaria desde luego amplia en relación con el almacén nuclear el número tres el parlamento vasco insta al gobierno de españa en funciones a no adoptar ninguna decisión administrativa y política ya está aprobado el gobierno

parlamento vasco insta al gobierno vasco a que traslade de manera inmediata la opción

eso no es nuevo en el debate parlamentario eso ya está aprobado

con la despolitización del consejo de seguridad nuclear debate muy interesante

que se puede estudiar allí donde corresponda pero ustedes no lo plantearon cuando se estudió y se conformó el consejo de seguridad nuclear ese debate en fin eso se puede estudiar tampoco es una cuestión

en relación con el cierre definitivo eso ya hemos visto que se ha aprobado otras veces lo hemos aprobado todos en esta cámara en otras cámaras incluso lo hemos impulsado algunos cuando teníamos responsabilidades de gestión municipal como el alcalde maroto

rojo estamos en un debate repetido estas cuestiones ya las hemos abordado

a debatir otras cuestiones usted tenía otra iniciativa mucho más interesante que esta en relación con esta cuestión y además no hubiese estado mal que la hubiese pospuesto para ver cómo hubiese quedado el panorama político después de estas semanas que vienen en relación

todo esto señora rojo ya lo habíamos aprobado muchas gracias eskerrik asko barrio jauna mistoa upyd maneiro jauna zurea da hitza

ya se ha dicho se trata de un asunto que ha sido debatido en este parlamento en los últimos años en infinidad de ocasiones la última vez que se debatió fue el pasado día diecinueve de noviembre no digo que debatir tanto de lo mismo

en otros debates porque además no hay demasiadas novedades sobre la cuestión además ya lo decía la señora rojo tres meses la central nuclear de santa maría de garoña es un clásico de este parlamento y sobre todo es un clásico cuando están cerca las campañas electorales esto mismo lo decía la señora rojo hace tres meses con lo cual da la sensación de que la señora rojo tiene información relevante en relación a una inminente convocatoria de elecciones generales porque efectivamente este es un asunto que

cuando están cerca las campañas electorales en todo caso ya digo que nosotros diremos básicamente lo mismo en esta ocasión

consecuencia de la reunión que el pasado día veinte de enero celebró el pleno del consejo de seguridad nuclear

al futuro de garoña recordando a este organismo que a día de hoy

de todos los asuntos de su competencia al margen de la coyuntura política de acuerdo a su condición de organismo regulador de la seguridad nuclear y la protección radiológica e independiente

posición del partido del partido socialista obrero español ni reabrir la central ni que esta sirva de almacén nuclear en un futuro es un posicionamiento como nos recuerda el grupo socialista y que nosotros evidentemente reconocemos

en este parlamento vasco y a la vista de las posiciones de los distintos partidos políticos con representación en el congreso de los diputados mayoritario también en el parlamento español siendo esto así y si todos ellos son coherentes y mantienen sus programas electorales es de suponer que será esa opinión mayoritaria la que finalmente impida la reapertura de la central nuclear

si esto es finalmente así aceptaremos dicha decisión con deportividad dicho esto que haya que admitir la posición política de la mayoría no puede impedir que los grupos minoritarios expongamos nuestra posición sobre la cuestión y en este sentido mantiene las mismas ideas que ha defendido en los últimos tiempos y que están recogidas también en esta enmienda de totalidad nosotros lo que proponemos es instar al gobierno de españa a mantener

todas las inversiones necesarias para que garoña pudiera si fuera el caso reiniciar su actividad

en todo caso toda la normativa europea de seguridad todos los requisitos técnicos y todas las exigencias internacionales creo que ahí también somos meridianamente claros

se tiene que reabrir cumpliendo absolutamente todas las exigencias de seguridad y toda la normativa española y europea y proponemos también como novedad en nuestra enmienda instar a los partidos políticos con representación en el congreso de los diputados a impulsar

de las principales instituciones del estado que deberían ser independientes de los partidos políticos y en concreto la despolitización del consejo de seguridad nuclear

en esa enmienda de transacción respecto al debate sobre la energía nuclear porque evidentemente hoy también debatimos sobre

nosotros pensamos como la consejera tapia que en el actual mix energético la energía nuclear juega un papel importante y que sigue siendo por tanto necesaria nosotros pensamos que un sistema con mucha energía renovable necesita una potencia garantizada de base que permita compensar los altibajos

de las renovables también los picos y los valles de la demanda o los fallos de otras fuentes

cumplen su función por esto defendimos que garoña cumpliendo todos los requisitos exigidos y todas las condiciones de seguridad que sean necesarias podía seguir funcionando por otro lado la energía nuclear tiene como toda fuente de energía aspectos positivos negativos aspectos positivos de la energía nuclear que también los tiene

o más barata que otras es una energía limpia o más limpia que otras es una fuente de energía que no emite gases de efecto invernadero como las renovables es una fuente de energía que no contribuye significativamente al cambio climático

que otras fuentes de energía estos son los aspectos positivos de la energía nuclear también tiene evidentemente aspectos negativos es una energía que está en general mal vista por la ciudadanía es una energía que está en cuestión consecuencia de que existe una sensibilidad social

es una energía que tiene sus riesgos cuando las centrales nucleares no cumplen todos los requisitos técnicos necesarios y es una energía que produce unos residuos

por lo tanto como todas las fuentes de energía también la energía nuclear tiene aspectos positivos y aspectos negativos que hay que poner encima de la mesa y sobre los que habría que debatir

por todo esto nosotros hemos venido defendiendo que la central nuclear de garoña cumpliendo rigurosamente todos los requisitos exigidos y todas las condiciones de seguridad que sean necesarias podría seguir funcionando y que evidentemente no puede seguir funcionando que tiene que

en el caso de que no cumpla todas las condiciones exigidas tan sencillo como esto creo que es algo que también podemos compartir una mayoría por otro lado

otros aspectos muy en cuenta garoña es una central que lleva parada tres años es una central que lleva tres años parada por razones económicas

o por razones técnicas es una central nuclear que tiene más de cuarenta años es una central que ha tenido en los últimos tiempos ciertos problemas técnicos que deben resolverse

sino que por razones económicas pero ha tenido ciertos problemas técnicos que evidentemente tienen que resolverse es una central cuya renovación la llevaría a una vida útil mucho más allá

y es una central cuyo mantenimiento puesta nuevamente en marcha provoca ciertamente rechazo social e incertidumbre en una parte significativa de la sociedad y también

además de todo esto durante los últimos años el gobierno de españa ha actuado con opacidad y falta de transparencia y llegó en su momento a crear normativa ad hoc para garoña lo cual no hizo sino enervar los ánimos antinucleares

un debate sosegado y razonado sobre la cuestión siendo todo esto así debemos exigir ser exigentes en relación a las decisiones que vaya a tomar el gobierno de españa debemos estar vigilantes para exigir

con la máxima transparencia y que la sociedad en su conjunto y también los partidos políticos reciban toda la información que sea exigible esto creo que también podemos compartirlo una mayoría de grupos de esta cámara puesto que sabemos como ha actuado el gobierno de españa

que los partidos políticos vascos queramos ser exigentes y estemos vigilantes en relación a las decisiones que se toman por lo demás ya digo mantenemos nuestra enmienda de totalidad instar al gobierno de españa a mantener todas las exigencias de seguridad

y todas las exigencias internacionales antes de decidir la reapertura de la central nuclear de garoña y si no cumple todos esos requisitos de manera rigurosa

esto es lo que defendemos y también planteamos la descolonización la despolitización del consejo de seguridad nuclear algo que finalmente hemos conseguido

aquí presentes incluyan en esa enmienda de transacción de hecho es la única novedad relevante de esa enmienda de transacción que ustedes han firmado señora rojo la única novedad relevante lo mejor que está recogido en esa enmienda de transacción

ya se ha probado nos alegra que por fin el partido socialista y el partido popular

que hay que descolonizar despolitizar las principales instituciones del estado y también el consejo de seguridad nuclear

en esta misma cámara se me llamaba antipolítico por defender este tipo de cuestiones bien ahora el partido socialista incluye en su enmienda de transacción la descolonización del consejo de seguridad nuclear por eso yo pediría la votación por puntos y evidentemente votaría a favor de ese quinto punto el resto no porque

plenamente en fin a continuación creo que va a intervenir

quiero decir antes de su intervención por aquello de animar un poco el debate que comparto fundamentalmente lo que el partido nacionalista vasco va a decir

la energía nuclear es necesaria a día de hoy y las centrales nucleares que no cumplan todos los requisitos técnicos deben cerrarse

la consejera lo planteó así en su momento creo que el gobierno vasco lo plantea también así y creo que es algo que podemos compartir con el partido nacionalista vasco la energía nuclear a día de hoy es necesaria y tienen que cerrarse definitivamente todas las centrales nucleares

los requisitos mínimos de seguridad creo que es algo perfectamente

más allá de grandes discursos nosotros y nosotras identificamos el escenario de la siguiente manera el pp dejó antes de las elecciones atado y bien atado como aventajados alumnos que son de de esta práctica

la mayoría necesaria para seguir manteniendo la actividad de la central la evidencia de que el pp quiere y siempre va a querer mantener garoña abierta aunque aquí en gasteiz y en araba digan lo contrario es evidente y se demostró hace unos pocos días en el congreso español

en madrid vota lo que les manda el partido y las empresas

el psoe aspirante al gobierno ha alcanzado un acuerdo con ciudadanos para el cierre definitivo de garoña

su nuevo socio ciudadanos haciendo gala del papel que está llamada a interpretar como vasallo de las grandes empresas no tiene nada claro el tema

pero no seremos dogmáticos y esperaremos al dictamen

gran dictamen y continuaba y analizaremos otros factores asociados

que es el coordinador que tienen sobre energía el uno de febrero el nuevo

como todos ustedes saben lo mismo que hacía el partido popular

antinucleares así que todo dependerá de si sánchez finalmente es nombrado

a ser bastante breve aun así es motivo de alegría

por su compromiso antinuclear y porque gracias a su lucha por fin parece que garoña puede cerrarse definitivamente

kontuan izaten badugu les hablo de interponer un recurso en contra del almacén nuclear que se planteaba abrir en garoña

las empresas energéticas dueñas de la central tienen mucho que decir y mejor no tenerlas enfadadas por ello declaraciones políticas sin problemas hechos concretos eso ya otro día hala ere

se podría abrir un periodo de cierta ilusión ya hemos vivido muchos

pero estos momentos siempre han venido acompañados de sus jarros

no sabemos si un posible gobierno de centro recentralizador y moderado llegará a cumplir con ese acuerdo si bien solo podemos exigirles desde aquí

sabemos que con el partido popular eso sería imposible aparte en los intereses de las empresas energéticas y primen los intereses y la seguridad

da el cierre de la central no será gracias a ningún gobierno de turno en madrid sino a la lucha de décadas de la ciudadanía esto no es un debate técnico es un debate puramente político si se cierra o no está en nuestras manos y sobre todo

que nos dicen que tanto pintan y en tanta estima les tienen en ese país vecino llamado

ez hartzera este es el texto de la enmienda del pnv

exige el definitivo cierre de las instalaciones de la central nuclear de garoña e insta al actual gobierno de españa a no tomar decisión alguna que facilite dicha reapertura

repetido en esta legislatura si hubiera que hacer un listado de los temas principales estarían en el pódium y ocuparía el primer segundo o tercer lugar pero yo creo que es necesario

seguir hablando de garoña por qué por oscurantismo hemos tenido que sufrir

el oscurantismo de la empresa privada que explota garoña y también el oscurantismo del consejo de seguridad

tres veces al año el asunto de garoña en este parlamento parece que no nos hacen mucho caso

estábamos aquí hablando de la posibilidad de un almacén temporal de residuos en garoña evidentemente dijimos que no se condenó ese almacén y sin embargo han pasado cuatro meses

era para almacenar residuos actuales de garoña si era para almacenar futuros residuos en un hipotético entrada en marcha de garoña

un almacén para utilizarlo para otro tipo de residuos nucleares de otras centrales na sabemos absolutamente nada

cada cuatro meses volver a la carga yo quería hacer

que evidentemente podrían sufrir un hipotético accidente nuclear

es la única tecnología que ha inventado el ser humano que se le ha revelado es decir el ser humano ha inventado técnicas aparatos industrias y todas medianamente

hidroeléctrica incluso una fábrica química no estaríamos hablando de eso porque sabríamos más o menos metidos en un posible accidente de una de esas

no tenemos ni idea para esto los ejemplos de siempre en chernobyl hubo un fallo técnico o un fallo humano y hubo un accidente nuclear y los ingenieros rusos no tuvieron mejor idea más brillante idea

en un sarcófago nuclear para que el generador nuclear y los residuos se quedarán ahí años más tarde paso lo mismo en fukushima y los ingenieros japoneses volvieron a repetir

todo lo enterrable pero sin saber cuantas décadas iba a tener que estar enterrado o tampoco sin conocer cuál era el futuro daño que podría provocar eso eso es como cuando estamos en la playa y cuando un niño hace caca pues que hay que hacer hacer un agujero con el pie

que no tiene ninguna sabiduría ni ningún remedio para hacerlo yo creo que esto no hace falta mucha imaginación para imaginarse lo que podría suceder

de vitoria gasteiz cuando hablamos del asunto de garoña al menos los nacionalistas lo hacemos sobre todo pensando no es si energía nuclear sí o no sino la energía nuclear producida por una central que tiene ya cuarenta años y que está completamente vieja y amortizada y en consecuencia por la seguridad o mejor dicho la inseguridad de las personas que viven a su alrededor hay que recordar que el reactor nuclear de garoña

le dio una vida útil de cuarenta años que ya ha cumplido ahora parece que quieren prorrogarlo un cuarenta por ciento más

a quién puede favorecer esta hipotética reapertura de garoña sabemos que la no se ha encarecido porque garoña se haya cerrado sabemos que

sabemos también que los beneficios de endesa e iberdrola tampoco han sufrido ninguna bajada espectacular porque garoña no funcione

un uno por ciento de su capacidad ese uno por ciento que evidentemente nadie ha echado

y desde el punto de vista energético y económico parece que no ha pasado absolutamente nada más es decir que el sistema eléctrico es capaz de funcionar sin garoña y puede evidentemente generar otras alternativas eléctricas al funcionamiento de esta central nuclear la pregunta es a quién la reapertura de garoña pues tenemos que concluir que quizás al gobierno del pp para demostrar

y en segundo lugar a la empresa privada que lo explota pero yo quería recordar que en un mundo quizás un poco más

fiar el beneficio de una empresa privada industrial

de iberdrola y endesa que podían ver unos centimitos menos de dividendo a final de año lo cual tampoco ha ocurrido también en el otro platillo de la balanza hay trescientos mil personas que viven alrededor de garoña y evidentemente tienen su seguridad condicionada

y a medida que la central envejece no se puede recauchutar una central nuclear podemos recauchutar un neumático podemos parchear una

un reactor que estaba pensado en cuarenta años no se le puede decir por arte de birlibirloque invierto cuatro pesetas tapo las fisuras y van a estar quince años produciendo más energía eléctrica hay que pensar

vivimos alrededor de garoña insisto nosotros también aquí en el parlamento vasco y en vitoria gasteiz

el de la seguridad de una central nuclear completamente amortizada no hay ningún otro argumento ni económico ni político

porque cuarenta años son bastantes y porque si se pusiera en marcha evidentemente afectaría gravemente a la seguridad de toda la gente

gracias presidenta existen infinitas razones para defender la ampliación de los permisos

y paternidad cada vez nos alejamos más de alcanzar un índice de fecundidad que garantice el remplazo generacional

una pirámide de población estable con todo lo que ello conlleva el índice de fecundidad en españa es de uno coma treinta y dos según datos de dos mil catorce las mujeres cada vez están menos dispuestas a tener hijos y es en parte por el coste de oportunidad

a la contratación femenina pero hay muchos más argumentos que los meramente relacionados con las cifras de contratación femenina y con la natalidad evidentemente y es que

tenemos derecho a disfrutar de ese momento irrepetible de la vida de nuestros hijos y de nuestras hijas es importante caminar hacia la verdadera conciliación que se alcanza tanto por el lado de los hombres como por el lado de las mujeres es importante caminar hacia una igualdad real

y mujeres y esto es difícil de conseguir cuando el permiso de paternidad es ocho veces menor que el permiso de maternidad manteniendo claramente el rol de la mujer

pero menos del dos por ciento disfrutó de las diez semanas que pueden ser transferidas

y menos del cinco por ciento de las excedencias no remuneradas o pagadas con tasas muy bajas fueron disfrutadas esto quiere decir que cuando el permiso es intransferible y remunerado los hombres hacen uso del permiso y por lo tanto esta es una medida que contribuye

y de las hijas esto es lo que defendemos nosotros en nuestro programa electoral impulsar la ampliación de los permisos parentales

para favorecer la igualdad de oportunidades laborales de hombres y mujeres

en la crianza de los hijos eso es lo que hemos recogido en nuestra enmienda de totalidad y evidentemente apoyaremos todas las medidas que vayan

esos objetivos es decir que defendemos la equiparación para los dos padres y madres de los permisos por nacimiento o adopción más allá de la recuperación física que la mujer que da luz al bebe necesita y que obviamente no puede ser compartida

que lejos de ser delegada debe ser compartida defendemos también la ampliación de este tipo de permisos hasta al menos los seis meses que recomienda la organización mundial de la salud es cierto que los permisos por maternidad y paternidad en españa

de la unión europea sin embargo existen países como noruega suecia islandia finlandia o incluso italia donde los permisos son mucho más amplios y se encuentran

de esos países y avanzar en esa dirección que creo que es una dirección positiva para todos y para todas el problema que nosotros vemos en la iniciativa original

sobre permisos que son regulados por leyes estatales y cuyo pago está gestionado por la seguridad social es

esta legislación única pretende mantener la igualdad en todo el estado y es por esa defensa de la igualdad en todos sus ámbitos

con un planteamiento que pretende romper la igualdad entre euskadi y el resto de españa o entre los funcionarios y el resto de trabajadores vascos

de la ley nacional por eso nuestra enmienda lo que hemos hecho básicamente es instar al gobierno de españa a cambiar esa ley quizás en las próximas semanas quizás en los próximos meses

defendemos esa posición de cambiar la ley nacional ya digo para impulsar el incremento y la equiparación de los permisos por nacimiento y adopción en todo el país de la manera más igualitaria posible por otro lado

piloto con derechos más aún cuando sabemos que esta es una demanda social que nadie rechazaría un derecho debe de gozar de garantías y no ser un experimento

los derechos deben extenderse mejor que experimentarse y es lo que defendemos modificar la ley nacional para que esos derechos se extiendan y lleguen al mayor número de personas por último queremos mostrar nuestro apoyo a la iniciativa legislativa de la plataforma

y adopción que el pasado diecisiete de febrero organizó

informativo en el congreso de los diputados donde presentó una muy interesante

para la igualación de estos permisos donde todos los partidos presentes en esa cámara acordaron consensuar una reforma integral de los permisos de paternidad y maternidad de forma que estos sean iguales intransferibles y pagados al cien por ciento estos tres principios

en el congreso se comprometieron a llevar adelante esta iniciativa entiendo que no habrá problemas para que efectivamente esto sea finalmente así y pasemos

por lo tanto que logre alcanzarse cuanto antes un acuerdo que haga efectivo este derecho al cuidado de los hijos y también el derecho de los niños y de las niñas a ser cuidados progenitores sin duda hay muchas cosas que hacer y esta es una de ellas nosotros en todo caso en principio mantenemos nuestra enmienda de totalidad acabamos de recibir una enmienda pactada entre eh bildu y el grupo socialista algunos de los puntos los compartimos como he explicado otros puntos

me dicen que no si esto finalmente es así nosotros lo que haremos será defender nuestra

perfectamente bien por otro lado lo que piensa supuestamente una mayoría de esta cámara nada más gracias eskerrik asko maneiro jauna

politika guzti hauek sustatzea dela una sociedad avanzada se caracteriza por tener políticas de conciliación avanzadas por tanto es obvio que todas las instituciones públicas administraciones públicas implicadas puedan tener

políticas encaminadas a la conciliación de la vida familiar laboral y personal de los padres

el asunto de los permisos de paternidad y maternidad por el cuidado de hijos e hijas adquiere un papel fundamental dentro de la conciliación

y familiar y es el debate que hoy se ha traído a esta cámara pero también hay que decir que no es la única medida

que contribuye a avanzar de forma efectiva en esas políticas de conciliación porque también hay que recordar aquí que los permisos duran lo que duran y que por muy amplios que sean están limitados

bultzatzea desde luego para avanzar en la igualdad y en la consecución de una igualdad efectiva entre hombres y mujeres es necesario

fomentar la conciliación de la vida laboral personal y familiar y desde luego para avanzar en la conciliación

es necesaria una implicación del sexo masculino

en muchos debates en los que hemos hablado de esta cuestión hemos hablado del papel que tiene que jugar la educación en el ámbito de la conciliación y más concretamente también en el ámbito de la corresponsabilidad

cuando hablamos de políticas de conciliación hablamos de políticas impulsadas en distintos ámbitos y me gustaría traer aquí a colación

todas aquellas medidas que posibiliten la paternidad la maternidad compartidas que se adopten en las condiciones económicas y sociales existentes y respondan

y al desarrollo afectivo psicológico y físico de los menores cómo no también el promover e incentivar que empresas sindicatos

se impliquen en la generación de una nueva cultura de trabajo que permita la conciliación y la corresponsabilidad como no

de horarios con los horarios actualmente existentes

y la cultura en general existente es muy difícil en muchas ocasiones compatibilizar la vida familiar y laboral porque hay que reconocer que aquí los horarios son más rígidos que en el resto de españa creo que en esta legislatura ha habido debates en el congreso de los diputados en el senado

importantes cómo no también hablar de las nuevas fórmulas de teletrabajo también que sin duda son medidas que posibilitan de forma clara avanzar en esa conciliación por todos compartida el debate que hoy nos ocupa es el debate de los permisos de maternidad paternidad ya se ha explicado las dieciséis semanas que corresponden a la madre la posibilidad de que el

seis semanas que serían irrenunciables de la madre y el permiso de paternidad

o hija a partir del segundo la previsión contenida en la ley de igualdad de las cuatro semanas que además hay que recordar que esta previsión

y sí que es cierto que los distintos gobiernos con responsabilidad en el gobierno de españa el primero de ellos que fue el que pudo desarrollar esta previsión normativa

pues no pudo llevar a efecto el cumplimiento de esta previsión como decía

prioridades de los sucesivos gobiernos y especialmente del gobierno del partido popular que fue el que se encontró una situación económica

pues ha hecho imposible la prioridad de la recuperación económica

el fomentar medidas concretas para el impulso del empleo han llevado a que la prioridad haya estado situada

radicalmente distinto al que se encontró en el año dos mil once

que hacer hincapié en esa consolidación de la recuperación económica y en la creación de empleo por lo tanto nosotros creo que también coincidimos porque además lo hemos manifestado así en todos los debates en avanzar en esa equiparación pero también entendemos

presupuestarias pues en estos momentos es un objetivo difícil

alcanzar en relación a la iniciativa original propuesta por eh bildu está claro que nuevamente incide en el ámbito competencial yo creo que cuando

helburua zein den la enmienda del grupo popular instaba

para avanzar en la conciliación y medidas también que dentro del ámbito competencial

en la paternidad y maternidad compartida que yo creo que también es el objetivo de todos los que estamos en esta cámara yo lamento que por parte de eh bildu y el partido socialista se nos ha pasado un texto

introducir alguna cuestión era bastante difícil sí es cierto que se nos ha entregado previamente al inicio

y se me ha trasladado esta mañana entiendo que ustedes han tenido una posibilidad de aproximación a lo largo de estos días

hemos intentado llegar a un texto de transacción con los otros tres grupos enmendantes pero también creo que ha habido un cerrazón por parte de todos incluso

en fijarnos más en lo que nos separa que en lo que nos une y yo creo que cuando hablamos de estos temas sería más conveniente fijarnos en lo que nos une que no en lo que nos separa que creo que es mucho por eso yo sí que voy a proponer

extensivo a todos los grupos incluso a quienes ya tienen la enmienda de transacción pero creo que sería bueno que podamos

en ampliar los permisos de paternidad y así poder favorecer la igualdad de oportunidades laborales también creo que sería bueno instar al gobierno vasco a que dentro del marco de la negociación colectiva adopte cuantas medidas y actuaciones sean necesarias dentro del ámbito de sus competencias para permitir la conciliación

y también instando al gobierno vasco a que se refuercen las políticas de conciliación existentes creo que también esto ha sido objeto de debate en esta cámara y en muchas ocasiones o en algunas ocasiones le hemos dado un pequeño tirón de orejas a este gobierno

que asumir las responsabilidades que le corresponden por lo tanto dejo abierto este texto que creo que es un texto de mínimos y que es un texto de mínimos que posibilitaría avanzar y poder sacar muchas cosas que nos unen más que las que nos separan en esta cuestión avanzar en un texto y que de esta cámara en este punto

consejera consejeros señorías buenos días el grupo eh bildu nos trae una reflexión que compartimos en general pero la justificación que se realiza en la proposición no de ley

a nuestro modo de entender y a nuestro juicio se queda un tanto corta porque en el fondo solo se proponen medidas para los empleados públicos que son los menos de los trabajadores y trabajadoras de euskadi

porque no hace referencia a los miles de hogares donde es un adulto sobre la inmensa mayoría mujeres

y a quienes esta propuesta no ofrece soluciones de conciliación y porque se centra solo en progenitores y se pasa por alto

más importantes hoy que lo será en un futuro atender los dependientes en distinto tipo pero la reflexión inicial la compartimos y creemos que esta realidad en que la mujer

no responde solo a una mentalidad patriarcal de hecho todos y todasconocemos aquí afortunadamente cada vez con más frecuencia que comparten de forma responsable las tareas de atención e hijas aunque no se apunten a esas excedencias quedan demasiados rastros de esa mentalidad sí pero sobre todo queda

y crece y se acrecienta la precariedad laboral entre ellas

quienes ocupan la mayor parte de los contratos temporales y a tiempo parcial y sería justo que también reconociéramos aquí que posiblemente hay más resquicios culturales que el hombre gane más que la mujer puede tener mucho que ver

con que sean ellas quien se cogen los permisos porque eso tiene menos incidencia en los ingresos de los hogares dirigidos a una pareja

por eso los socialistas creemos que hay que actuar en todos los frentes

y sí como señala la proponente hay cosas que no están directamente en las manos del gobierno vasco efectivamente pero sobre las que

hay propuestas concretas que si hay un gobierno socialista son posibles porque la propuesta del psoe a los distintos partidos

de la igualdad salarial y el aumento de los permisos de paternidad en términos muy similares

hay otras cuestiones que sí están en nuestra capacidad de decidir

de que pueda a ver decisiones extensivas al resto de españa y sí son las que planteamos en nuestra enmienda algunas ya las introdujimos

como es el teletrabajo en todos los ámbitos de la administración

que sigue en vigor y al que parece que se han acogido en el último año un centenar de empleados públicos es una fórmula que se puede también trasladar

a patronal y sindicatos para explorar en los puestos de trabajo donde sea posible también se puede trasladar en este ámbito de diálogo social fomentar en las negociaciones colectivas la racionalidad de horarios

establecer créditos de horas para atención de familias por igual para hombres y mujeres sin que esto a sus salarios y tenemos que pensar en esas nuevas formas de familias la proponente cita una realidad la de la pareja homosexual su reconocimiento legal en todos los ámbitos

en igualdad con cualquier otra forma de elección ha sido una conquista sin duda y se tiene que reflejar también en este ámbito en la conciliación

fruto también de la larga lucha por la igualdad y que también

amparo en la conciliación ni con otra serie de necesidades especificas

a los ochenta mil hogares monoparentales de euskadi la gran mayoría

son hogares donde una mujer en solitario se hace cargo de la atención de sus hijos e hijas por distintas razones

la maternidad en solitario y en mi grupo nos preguntamos cómo pueden ejercer la conciliación real esas personas en solitario

al que debemos dar más respuestas pero que hoy hablamos en concreto hay una cuestión

y a la que el gobierno no ha dado respuesta

de paro y pobreza de noviembre del dos mil catorce a instancias de nuestro grupo el grupo socialista

un plan especifico de apoyo para las personas trabajadoras que

o paradas y que tengan cargas familiares de forma que puedan asistir a cursos de formación imprescindible para su reciclaje

en todo tipo de trabajadores y desempleados con cargas familiares pero que pensábamos específicamente en quienes no tienen con quien compartir

como ya anteriormente he explicado que repito están encabezadas especialmente por mujeres y que son además especialmente vulnerables y con riesgos de exclusión este debate que nos ha traído

nos ha parecido una oportunidad para que el gobierno recuerde que debe cumplir también

a las posibilidades de conciliación y a la lucha contra las distintas formas

por ello los socialistas estamos a favor de comenzar a equiparar los permisos por nacimiento y adopción de niños y niñas si es preciso por mandato legal no solo esto en debates anteriores

a que la conciliación sea un derecho subjetivo a la conciliación no las ayudas sino la conciliación en sí que esté

sin que esto nos penalice especialmente a las mujeres en nuestra vida laboral y en nuestra trayectoria profesional creemos

el de la protección de los derechos sociales desde criterios de solidaridad y desde lo público

y sí podemos empezar por hacer lo que está en nuestra mano la administración pública vasca con medidas de flexibilidad en el trabajo

en los puestos públicos donde sea posible implantarlo fomentando el acuerdo social y la negociación colectiva

a perder sus empleos ni su bienestar para que

atiendan también a sus dependientes en especial a los mayores en una euskadi que cada vez está más envejecida

no sigan haciendo malabares para ocuparse de sus allegados

lo suponga riesgos de exclusión por tanto apostamos que esta igualdad que debe reforzarse aún en el ámbito legal

en mayor medida al trabajo y cuidado doméstico y que participen plenamente

tanto de hijos e hijas como familiares enfermos o con alguna discapacidad apostamos por seguir trabajando cambios en las actividades de género hacia un modelo

fomentando conductas más igualitarias tanto en el hogar como en la pareja apostamos por que esta conciliación sea posible en nuevas formas de familia fruto de la libertad

se puedan desarrollar sin excusas por nuestra parte apostamos por cambiar las bases mismas de desigualdades en las que parte de las mujeres mediante

para el conjunto de españa pero también por cambiar lo que está aquí en nuestra mano no solo para empleados públicos sino para el conjunto
de trabajadores y trabajadoras muchas gracias eskerrik asko fresno andrea

aprobó el proyecto de ley de empleo público vasco cuyo objetivo es actualizar el sistema de empleo público regulado hace veinticinco años en la ley de función pública

vigente desde el año mil novecientos ochenta y nueve y entre novedades eleva de dieciocho a veinte semanas el permiso de maternidad

no es equiparar no que es lo que desde luego a mi grupo parlamentario y a este gobierno le gustaría pero son pasos hacia adelante pasos hacia su consecución

lo curioso es que allí donde es competente para hacerlo en madrid

fue el primero quien incumplió esta premisa de avanzar hacia la consecución de esa equiparación y así desde el año dos mil nueve hasta día de hoy

es el título del acuerdo que se está fraguando estos días entre el partido socialista y ciudadanos punto cuarto punto tres del acuerdo medidas por la igualdad entre hombres y mujeres dice

así como el establecimiento de fórmulas de disponibilidad horaria que permitan a los trabajadores y trabajadoras acumular créditos de horas para la atención de responsabilidades personales acumulado

deben analizarse y encauzarse mediante la negociación colectiva que es lo que mi grupo solicitaba en su enmienda y después también

pasando de las dieciocho semanas actuales a veintiséis el permiso de maternidad intransferible se ampliará de seis a ocho semanas el permiso de paternidad será de ocho semanas intransferibles la distribución de las diez semanas restantes será opcional entre la madre

como vemos en el ámbito en el que es competente esta cuestión puede haber muchos cambios cambios para bien en el camino de la consecución de la equiparación de bajas por maternidad y por paternidad no es ningún secreto que el partido al que pertenezco anhela y exige la transferencia en materia de seguridad social pero mientras que eso no ocurra debemos atender la cuestión de manera realista y siempre buscando el bienestar

si este acuerdo suscrito por el partido socialista y ciudadanos fuera efectivo y la seguridad social se hiciera cargo de esas ampliaciones y permisos planteados este gobierno el gobierno vasco

ya lo está haciendo tal y como refleja el proyecto de ley presentado pero tendría margen para ir mucho mas allá porque la equiparación no es el motivo de discusión hoy aquí no es el desencuentro el modelo cuál es el mejor modelo para instaurar esa equiparación aquí en euskadi

sí bueno quería preguntarle a bildu si es su modelo el que el propone es el mejor no me está escuchando

es el mejor para euskadi podría dar cabida a nuestras necesidades

esa y muchas más porque hay muchísimos modelos

y no sabemos cuál de ellos sería el más apropiado para nosotros experimentos como ha comentado el señor maneiro me parece que no es el momento de hacer ningún experimento

todas ellas y por supuesto que emakunde tiene mucho que decir emakunde al igual que otros muchos agentes pero dentro del marco de la negociación colectiva que es lo que siempre

que se puede proponer cosas bien pero por qué tiene que ser justo ese única y exclusivamente

no hay ningún análisis previo que lo indique en la argumentación se dice que es el adecuado porque en islandia ha ido bien muy bien y esa es una prueba inequívoca de que es la solución más idónea aquí el modelo islandés obliga al padre a cogerse un tercio del permiso es eso lo que queremos que solo

eso de verdad va a asentar las bases de la corresponsabilidad tampoco es un cien por ciento remunerado

hay infinitos informes hablando de este tema y no entendemos por qué

de negociación colectiva o al gobierno a que ponga en marcha esa única y exclusivamente porque a bildu le parece la mejor

un titular y eso es una equivocación es una equivocación predefinir cuál va a ser el camino y décimos de cara a la galería sobre todo echando un vistazo a la transaccional firmada

ahora le corresponde a españa al gobierno central

porque ese proyecto piloto es la única opción posible y que emakunde analiza situaciones de desigualdad de las mujeres por su dedicación a la atención de menores independientes

lo viene haciendo desde hace muchísimo tiempo no podemos asumir este punto y el resto de puntos a instancias del partido socialista pues más de lo mismo si es que en todas ellas el gobierno ya está trabajando me parece haberle entendido señora fresno que es que encima son propuestas del partido socialista en el acuerdo ya se está trabajando en ello

ahora mismo tenemos

en este ámbito un marco jurídico amplísimo a nivel estatal y a nivel de euskadi y creemos importante que es el momento de alcanzar acuerdos firmes y progresistas efectivamente pero eficaces y realistas sin condicionar a todos